gracias señora presidenta señor lehendakari miembros del gobierno

popular a la firma de este convenio entre la administración general de la comunidad autónoma de euskadi y las diputaciones forales

del convenio que se pretende apruebe la cámara hoy no es otro que el de implantar y desarrollar una serie de unidades didácticas

secundaria de todos los centros escolares de los tres territorios forales vascos en el que se enseñe

territorio es decir de dónde viene el dinero público cómo se distribuye entre nuestras administraciones y en qué se gasta ese dinero público todo ello

de un plan que se estableció ya hace tiempo de lucha contra el fraude fiscal obviamente ante esto el partido popular no se opone todo lo contrario

entendiendo que es fundamental que precisamente sean los más jóvenes quienes para evitar esa distracción fiscal que puedan tener cuando sean adultos y cumplan directamente sus obligaciones tributarias tengan un conocimiento claro

de esta parte del convenio el grupo popular no tiene nada que decir sino reitero todo lo contrario insistir en que existan más proyectos como este

la hacienda foral guipuzcoana desarrolló hace un tiempo que ya ha invertido un dinero en sacarlo adelante y que pone a disposición de los otros territorios

salvaguardar igualmente como recoge el convenio las peculiaridades de cada uno de los tres territorios en materia tributaria para que puedan desarrollarse en cada uno de sus portales webs incidiendo en esas pequeñas diferencias que existen

del convenio es aquí donde surge la discrepancia de nuestro grupo

el gobierno se propone que el cincuenta por ciento de los gastos que suponga el desarrollo de este currículo y su implantación

anuales como máximo corra a cargo la mitad del gobierno vasco y la otra mitad de los tres territorios forales conforme a los coeficientes que

la normativa de distribución de nuestros ingresos y es ahí donde surge efectivamente nuestra oposición con qué base jurídica nos dice el convenio que se hace pues muy sencillo porque dice que los tres territorios históricos tienen la competencia de hacienda y de materia tributaria

nos dice que la competencia de educación corre exclusivamente a cargo del gobierno vasco

es una materia económica y tributaria le corresponde pagar la mitad a las diputaciones y como se hace dentro del marco de la enseñanza obligatoria le corresponde la otra mitad a educación del gobierno vasco

la competencia de educación es exclusiva del gobierno vasco eso no quiere decir que todo lo relativo a educación

directamente habrá otras cosas en las que tendrá que colaborar pero no en la financiación de convenios como este y menos como ya ocurrió en su momento cuando se empezó a desarrollar el sistema o a poner en práctica esta idea ya por el año dos mil trece dos mil catorce

este tipo de proyectos entendemos que tanto gobierno vasco como las diputaciones forales tienen medios personales y técnicos suficientes y necesarios para

el objeto de este convenio y que siendo una competencia única y exclusiva del gobierno vasco debe ser él quien corra con todos los gastos yo no me imagino si en el próximo ejercicio

se decide que se va a implantar un módulo a los centros de primaria para explicar las peculiaridades de nuestro clima y nuestros montes y que como eso es una

a tener que financiar a partes iguales entre las diputaciones forales y el gobierno vasco carecería por completo de sentido enseñar la geografía o enseñar nuestras peculiaridades administrativas o en este caso tributarias es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno vasco por eso entendemos que la financiación debe ser al cien por ciento

de educación sé que las cuantías son muy pequeñas y también sé que esto se ha venido haciendo

es cierto pero eso no quiere decir que esté bien hecho ese viejo argumento de que si siempre se ha hecho así es muy propio de la administración pues nos puede llevar a equívocos a irregularidades

a asuntos que se han llevado desde un principio por un error perpetuado en el tiempo

simplemente queremos poner de manifiesto que cuando sean competencias propias de una administración debe ser esa administración quien corra con el cien por ciento de los gastos en aquellos casos que las competencias de alguna manera se vean compartidas o que sean

a diferentes competencias de distintas administraciones es entonces cuando debe claramente convenirse entre las distintas administraciones no solamente la forma de implantar o desarrollar los proyectos sino también de financiarlos

a este proyecto es por el que hemos planteado la oposición y solicitamos al resto de los grupos que nos lo apoyen muchas gracias eskerrik asko

tampoco a vosotros todavía no hemos empezado la votación no le he dado

pero sabemos qué es lo que votamos primero no vale

aldekoa sesenta

para nosotros para los socialistas la educación fiscal es un motivo no poco importante porque nos parece que no solamente una regla matemática de aplicación de impuestos

oneroso que cumple la ciudadanía es mucho más es una forma de entender el estado de bienestar es una forma de entender que los impuestos no son una carga ciudadana son un método de redistribución de riqueza de compensación de desigualdades y de sostenimiento del estado de bienestar

con el partido nacionalista vasco y posteriormente se sumó el pp nos parecía que este asunto era uno de los asuntos importantes aunque esté relacionado también con la lucha contra el fraude fiscal

de ese mismo modo planteábamos que esa propuesta

y en convenio con las tres diputaciones forales que hoy por hoy tienen la competencia tributaria para regular los tributos de ahí viene este

entender la postura contraria de su partido a este convenio porque el convenio ha sido firmado entre el gobierno vasco

y gipuzkoa y puestos a poner en la balanza entre la importancia

que ponga en valor lo que tiene de solidaridad con todos especialmente con los que menos tienen la política fiscal se pone más peso en la balanza

creo que en peso en importancia política y en calado de la iniciativa es evidente que pesa mucho más la creación de una unidad didáctica sobre educación fiscal el que nuestros jóvenes conozcan para qué sirven los impuestos

de llegar dinero a las administraciones públicas es una forma de solidaridad de justicia social y sobre todo de redistribución de riqueza así se creó la europa del bienestar que conocemos todos después de la segunda guerra mundial y es algo a lo que creo que no debemos renunciar

donde se debatió esa propuesta de creación de la unidad fiscal votaron a favor del establecimiento de esa unidad didáctica por eso no acabamos de entender que por una cantidad

el partido popular se pueda oponer a la formalización de este convenio

el pasado uno de marzo de dos mil diecisiete desde elkarrekin podemos registramos una proposición no de ley en relación a la educación fiscal donde instábamos

consensuando los contenidos adecuados con la comunidad educativa en la educación sobre el sistema fiscal y los servicios públicos y por otro lado instábamos al gobierno a adquirir el compromiso de establecer de cara al curso dos mil diecisiete dos mil dieciocho

proyectos firmes y adecuados a todos los niveles educativos esta iniciativa se debatió en la comisión de educación el treinta de mayo pero curiosamente dos días antes el veintiocho de mayo el gobierno vasco representado por el consejero de hacienda y economía

y gipuzkoa presentaron un proyecto compartido de implantar un módulo educativo cívico tributario en los centros de la comunidad autónoma de euskadi

tal y como expusieron en la rueda de prensa la iniciativa se enmarca dentro

y parte de la experiencia que viene desarrollando durante los últimos años gipuzkoa en los centros escolares del territorio hace año y medio la consejera

anunció que el alumnado vasco de primaria y secundaria iba a trabajar la conciencia y la educación fiscal desde entonces el departamento de educación no se ha hecho cargo del timón como debía

no se ha hecho un proyecto real no se ha desarrollado unidad didáctica alguna

en materia de fiscalidad y administraciones públicas sin embargo hemos de decir que aunque la firma de este convenio nos parece una buena acción sinceramente para promover como valores de la sociedad la participación en el sostenimiento de los servicios públicos y la tolerancia cero

vemos una incoherencia en ello por qué primero porque no es coherente

acerca de la importancia de ser consciente de nuestras obligaciones fiscales y al mismo tiempo no luchar

condonar las deudas tributarias o cubrir la opacidad de la información sobre los grandes defraudadores y en segundo lugar porque no es coherente

y al mismo tiempo no aceptar las recomendaciones de las personas expertas en lucha contra el fraude y no dar ejemplo por ejemplo permitiendo la existencia

o no permitiendo en esta misma cámara la creación de un observatorio independiente contra el fraude fiscal no estamos en contra de que se imparta esta tipo de formación al alumnado ni mucho menos y lo vemos

ética pero sí nos preocupa que estas iniciativas se utilicen para hacer mera propaganda por otro lado nos hubiese sido interesante nos hubiese parecido interesante

hasta el momento en dicha materia y así ayudar a su mejora asimismo vemos bien y nos parece positivo trabajar

las diferentes administraciones de la comunidad autónoma de euskadi pero nos hubiese gustado que el departamento de educación hubiese liderado los contenidos educativos al objeto de que el alumnado asuma sus deberes

de los bienes comunes y de nuestro sistema del bienestar valorando la participación individual

la solidaridad y la redistribución como elementos de cohesión social

comprometido con un desarrollo social justo y sostenible por otro lado en cuanto al contenido de la unidad didáctica detectamos falta de contenidos en relación

observamos que las distintas opciones sobre fiscalidad se presentan al alumnado descontextualizadas y sin presentar el marco teórico que sustenta cada una de ellas y por último y no por ello menos importante nos hubiese gustado que el gobierno vasco hubiese adquirido el compromiso de asegurar que en el diseño de los contenidos de dichas formaciones se cuente con la colaboración de la red

con el fin de ofertar al alumnado una formación en materia tributaria y fiscal que contemple todas las alternativas posibles en definitiva

y no vemos problema alguno que sea un proyecto financiado por

todas las instituciones de la comunidad autónoma de euskadi eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna ubera andrea zurea da hitza

horren balioa tiene tres claves muy importantes la forma de trabajar de ese grupo cooperar colaborar y coordinar la coordinación corresponde al órgano de coordinación tributaria que de ahí le viene el nombre

hacienda del gobierno vasco cooperan las tres diputaciones forales porque cada una en el ámbito de competencias de su territorio desarrolla distintas líneas de actuación

en este ámbito de la lucha contra el fraude fiscal pero además colaboran de forma conjunta de modo que cada una de ellas aportan sus experiencias positivas que cuando cuentan con el apoyo o el ok el visto bueno del resto de administraciones competentes se incluye también poder extender e implantar las propuestas en todo el territorio todo en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal cada una trabaja y trabaja mucho cooperan

y entre otras cosas este es un programa que se va a hacer de forma conjunta además incluyendo un nuevo agente a la colaboración que es el departamento de educación del gobierno vasco por lo tanto en cuanto a lógica y metodología de funcionamiento es un modelo a seguir horretaz gain esanguren neuskizu

esa pregunta tan normal y frecuente hoy en día de

señorías presentamos en este turno la moción consecuencia de la interpelación que presentábamos hace quince días en esta cámara

o de no entendimiento entre las juntas administrativas que tienen instalados en sus montes públicos centros de telecomunicaciones y la empresa y el gobierno vasco empresa itelazpi cien por ciento pública dependiente del gobierno vasco que es la gestora de estos centros el conflicto viene

el desacuerdo viene fundado porque las juntas en sus plenos derechos y competencias quieren regularizar esta situación y lo que es habitual que las juntas hagan

podemos hablar de setas podemos hablar de colmenas

tiene un canon cada junta establece los cánones sí que está supervisado y asesorado por diputación y la pregunta que se hacen las juntas es por qué no estos centros que están ubicados

relato de unos cuantos años de relación y de no vamos a decir conversaciones sino cambio de documentos entre juntas diputación

donde no se ha llegado a un acuerdo y se ha llegado más bien a un conflicto que en algunos casos

y se ha judicializado y entendemos que la relación tiene que ser otra ustedes

la semana anterior aquí la interpelación ha habido comparecencias en comisión tanto desde de itelazpi como la presidenta de la junta administrativa de ariñez que fue la que más ha peleado por

reconducir esta situación efectivamente como les decía siempre ha sido complicado transmitir fuera de álava

sus derechos cuáles son sus competencias cuál es el arraigo que tienen y es que es muy importante el arraigo que tienen en álava las juntas administrativas y no ha sido fácil

en otros a la hora de desarrollar planes sectoriales a

competencias el agua pues ura no entiende a veces que las juntas administrativas

por lo tanto llegado esa situación y vistos los distintos informes que también la diputación foral de álava ha emitido respecto a este asunto donde decía que itelazpi debe contar con la autorización

donde se asientan las infraestructuras de telecomunicaciones y además decía otra cosa estos informes que debe abonar un canon por dicho uso según la norma foral de montes norma que se aprobó

pero es que también tenemos una ley del dos mil tres de telecomunicaciones donde dice que no revisten el carácter de servicio público las telecomunicaciones

civil el gobierno se ha mostrado un tanto rebelde a entrar en cómo resolver esta ocupación y es curioso que las empresas vinculadas al gobierno vasco y los departamentos que tienen

a la vez que itelazpi paga un canon al gobierno vasco porque tiene

fueron transferidos en su día pero es la instalación la infraestructura no el suelo

pagan un canon pero no paga un canon por el suelo

decía suelo de monte público que para otros servicios sí se paga un canon

desarrollar en un monte público y todos tienen una tasa o canon por lo tanto nuestro interés y creo que ya ha quedado claro a lo largo de las diferentes intervenciones que hemos tenido en esta cámara

es que se llegue a un acuerdo y a un convenio con las juntas administrativas donde estén ubicados

estos centros de telecomunicaciones para llegar a una buena relación normal

decir que se presentó una proposición no de ley se presentó una moción se han hecho enmiendas

importante porque hemos pasado de esa rebeldía del gobierno mostrada durante todo este tiempo a estar en predisposición de sentarse a una mesa y negociar no ir directamente a

sentarse a hablar y creo que hemos pasado como les decía de ese no quiero saber nada o yo me mantengo en mis trece a vamos a hablar vamos a

yo entiendo que seguramente las juntas administrativas quisieran más quisieran que hoy de aquí

un casi un preconvenio ya con todo marcado porque llevan mucho tiempo detrás de esto y quieren ya un resultado firme

que se entienda su petición pero bueno yo creo que hemos avanzado y todos los avances en este tema son desde nuestro punto de vista positivos decir que hemos llegado a una enmienda de transacción que nos parece importante

a fin de lograr un acuerdo entre las entidades locales alavesas la diputación foral de álava y la empresa pública itelazpi que respetando las competencias normativas que cada entidad tiene atribuidas

los montes de titularidad de las entidades locales concejos y establecer los requisitos y condiciones de dicho uso incluyendo una contraprestación económica dicho acuerdo detallará los derechos y las obligaciones de cada parte

que cada parte deberá asumir por el buen desarrollo del servicio decimos también que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que indique a la sociedad pública itelazpi

los concejos conozcan quiénes son los usuarios de los espacios y pongan

que permitan el acceso a la información lo cual se enmarca dentro de los principios de transparencia y publicidad que deben inspirar la actuación de las sociedades públicas esto no se daba parece mentira pero una empresa pública que está ocupando un espacio que no le corresponde y que es de otra administración

no sabe el concejo qué está ubicado en ese espacio

hay otras empresas que ocupan espacios de montes públicos que cada vez que tienen una actuación

comunican se comunican es algo lógico bueno aquí no se daba este caso si hay que hacer una torre más para albergar otros espacios nunca se ha comunicado ni a la junta administrativa ni al ayuntamiento porque también los ayuntamientos tienen aquí unas funciones que son las licencias de actividad que es

creo que es importante y me cuesta tener que recordarlo aquí y ponerlo en un papel pero es que no se daba por lo tanto

este paso también va a marcar un antes y un después en las relaciones entre itelazpi las juntas administrativas los ayuntamientos y la diputación y también el gobierno

y a la empresa pública itelazpi a tratar de evitar judicializar el acuerdo alcanzado una vez se produzca haciendo una apuesta clara por solucionar las desavenencias en la interpretación del mismo o en los desacuerdos que puedan surgir mediante el empleo de soluciones alternativas como la mediación y el arbitraje y

lugar el parlamento vasco insta a las instituciones implicadas y a la empresa pública itelazpi a analizar la posibilidad legal de que el pago de la contraprestación económica que se acuerde tenga carácter retroactivo

de retroactividad a aplicar no quiero detallar ya más asuntos porque creo que como les decía en las distintas iniciativas que ha habido en este

en torno a itelazpi se han recogido lo que es el histórico de esta situación lo que cada uno hemos aportado en esos distintos debates y lo que nos corresponde ahora es poner en valor el acuerdo yo quiero agradecer de verdad

de los grupos que apoyan al gobierno el apoyo y el trabajo que han hecho para llegar a este acuerdo que nos parece importante igualmente a eh bildu y a podemos porque cada uno nos hemos dejado nuestras cosas

propiciado entre todos que este acuerdo vaya adelante por lo tanto lo que nos queda ahora es que este acuerdo se cumpla y que llegue a buen fin y que todas las partes

sí ahora gracias señora presidenta como está acumulada la moción y la proposición no de ley hemos llegado a un acuerdo

habría que votar primero la moción y luego el acuerdo que hemos llegado por lo tanto retiro la moción y votamos solamente la enmienda de transacción

y quiero destacar la sensación de soledad la sensación de poca colaboración institucional la sensación

que nos transmitió la comparecencia del otro día la persona que vino a hablar en nombre de

estuviera en el centro del debate y que al día de hoy todavía estaba pidiendo explicaciones cuando en realidad lo único que había hecho

defender los derechos de sus vecinos y de sus vecinas los derechos que sus vecinos y sus vecinas tenían eta nik uste dut hau aipatu behar dugula oso gauza

aipatu genuen esan genuen la posición de euskal herria bildu es que esto solo se puede solucionar mediante un acuerdo nos ponemos a disposición de todas las partes para lograr ese acuerdo y la verdad es que ese ha sido el trabajo que euskal herria bildu ha hecho ha hablado con las entidades locales ha hablado con los concejos ha hablado con los diferentes partidos de esta cámara y ha intentado buscar un acuerdo que solucione el problema que había porque entendíamos que

y evidentemente en ese acuerdo era necesario también que el gobierno vasco tuviera algún tipo de implicación porque itelazpi no deja de ser una sociedad pública que está participada en su totalidad por dinero público y por intereses públicos

bere jarrera izan da akordioaren aldekoa hasieratik pero tenía unos puntos rojos que le hacían difícil llegar al acuerdo pues bueno había una discusión en relación con cómo se tenía que hacer esa contraprestación

se supere bueno porque creíamos que era bueno

que porque quedarse fuera de la manta del acuerdo parlamentario en un tema como estos pues lo que hacía es dejarla a usted con mucho frío a pesar del calor que hacía fuera y entonces

ni los alcaldes del partido nacionalista vasco que están y conocen todo esto pues iban a entender una postura de esa forma a mí me da igual la razón a mi lo que me importa es que hemos conseguido este acuerdo y que hemos conseguido traer las aspiraciones que todos y todas teníamos

el propósito que desde el inicio teníamos es verdad que desde el principio hemos tenido colaboración de podemos y del partido popular

yo le agradezco su colaboración le agradezco su predisposición le agradezco todo sigo sin entender que ustedes no firmen

le falta un poquito para mejorar a ver si conseguimos mejorar en octubre en cualquier caso también muy muy agradecidas

sino los concejos y las entidades porque hemos conseguido este acuerdo eta amaitzeko gauza bat argi daukat gu adi egongo garela gu

que nadie piensa que es una amenaza es simplemente una advertencia

vigilantes para el cumplimiento de esto porque creemos que es bueno para todas las partes

de que este tema se cierre con un acuerdo satisfactorio para todo el mundo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia

el primer punto del acuerdo refiere a materializar un acuerdo entre las entidades locales alavesas

de uso de los espacios ocupados por las antenas por las torres

la contraprestación económica que es donde está una de las grandes partes de la cuestión el meollo porque al fin y al cabo es importante señalar que

entidades locales para las cuales obtener la prestación o no por el uso de su monte supone una gran diferencia también el tercer punto llama a y trata de evitar la judicialización de los acuerdos establecidos a nosotros nos gustaría que directamente

precedentes y existe esto ya ha sucedido como el recurso que interpuso itelazpi y el que interpuso el gobierno vasco contra la orden foral cuatrocientos setenta y uno barra dos mil catorce de treinta y uno de octubre trataba de regularizar la ocupación del repetidor ubicado en zaldiaran una orden foral que fue anulada por la caducidad del procedimiento la junta administrativa de ariñez que es la

la regularización de la ocupación por el uso privativo del monte de utilidad pública el servicio de montes de la diputación de álava y la asesoría jurídica han empezado otra vez ya a trabajar o empezaron a trabajar en la redacción de una

regularizar la ocupación del repetidor al considerarse una utilización privativa

al titular de ese monte y por tanto sujeta a concesión administrativa fijando

de esta ocupación en el caso de kontrasta también otra junta administrativa afectada otro concejo afectado por esto igualmente se hizo una orden foral

anterior son el comienzo de otros muchos ayuntamientos o juntas administrativas que tienen el mismo problema

más lo es que la mayoría de estos centros de telecomunicaciones no cuenten con la autorización correspondiente de la diputación foral

en araba de los treinta y tres repetidores solo uno cuenta con este permiso que es concretamente el de aspárrena por el centro emisor de araia siendo al único al que se paga

los treinta y dos restantes repartidos por toda la geografía alavesa no disponen de la correspondiente autorización administrativa de las diputaciones forales si no me equivoco

cuentan con las condiciones legales correspondientes la cifra de los centros de telecomunicaciones sin autorización alcanza los cuarenta y cinco itelazpi sí que

según su propia memoria la cifra del negocio el año pasado se elevó a doce coma seis millónes de euros

si tenemos en cuenta la del director de itelazpi que cuando compareció aquí planteó una percepción sobre lo que es una empresa pública que nosotros desde luego no compartimos no compartimos desde luego el hecho de que

permita usar sin ningún tipo de condiciones el terreno público pero tampoco compartimos el hecho de que el servicio que estas torres están dando es público porque no lo es planteaba el director de itelazpi que la ley obliga a las compañías de telecomunicaciones a cubrir unos mínimos de cobertura y planteaba o así yo entendí

convierten a estos servicios en servicios públicos nosotros obviamente no compartimos eso porque evidentemente son servicios que ofrecen empresas privadas que pagan por la utilización de las torres y generan ingresos a itelazpi por esta utilización y que luego se benefician económicamente del negocio que tienen del cual esta red de telecomunicaciones es parte para itelazpi

contempla el seguir manteniendo la actividad de forma gratuita porque no hay utilidad económica para el concesionario obviando como ya he dicho que el servicio de telecomunicaciones

siete meses y trece días de espera pudieron acceder al centro emisor realizando una inspección que evaluaba en un millón trescientos cuarenta y tres mil los ingresos anuales

como ya he dicho antes itelazpi omite en sus manifestaciones o lo planteado

que a partir de la ley treinta y dos barra dos mil tres las telecomunicaciones no revisten en carácter de servicio público salvo para la defensa y la protección civil y además como ya se ha dicho también la norma foral de montes la once barra dos mil siete de la diputación foral de álava

ni siquiera para concesiones de interés general declaradas por el estado

es paradójico además el no abonar a las juntas administrativas mientras que itelazpi abona un canon anual al gobierno vasco y que empresas vinculadas al ejecutivo para a itelazpi por los servicios prestados por esta

con las cifras de negocio que llevan a cabo recurra el canon de ocupación del suelo que nos suponía unos veintiuno mil euros para la junta administrativa de ariñez exigiendo la devolución de lo cobrado y las costas del juicio

la verdad es que suponen un ejercicio de soberbia intelectual un abuso de poder

era necesario reconocer por el gobierno vasco el canon o la contraprestación económica que se deben pagar

este concepto esté presente en el punto uno incluida además la retroactividad de estos pagos si legalmente así fuera posible

porque evidentemente los juicios son malos para todos hay que definir criterios de valoración para evitar que los tribunales entiendan que son criterios injustificados ya se alcanzó un acuerdo al respecto en las juntas generales de araba y nos alegramos también que se haya alcanzado un acuerdo hoy aquí

como ya se ha dicho y como ustedes saben itelazpi es una empresa cien por ciento pública es una empresa que sus presupuestos forman parte de los presupuestos de la comunidad autónoma del país vasco y por lo tanto es una empresa que tiene un interés público

esencial y que además presta algunos otros servicios itelazpi no es una empresa que esté funcionando por su cuenta y riesgo y al margen

o convenio entre instituciones aunque efectivamente ese cuadro de relaciones institucionales no está completado pero habrá que recordar que en el año dos mil ocho ya se hizo un convenio entre el gobierno vasco y las diputaciones forales para tratar de que una red que empezaba a generar

síntomas de cansancio en cuanto al sistema de comunicación

que es lo que en estos momentos se dedica itelazpi

itelazpi además de garantizar que las comunicaciones lleguen a todos los lugares es decir a todos los ciudadanos y ciudadanas del país vasco hace servicios que no solamente son esenciales que no solamente son públicos sino que también son privados es cierto que por ejemplo las televisiones privadas tienen una capacidad de cobertura a todos los rincones del país no porque hayan invertido en ella ya que la ley les obliga a una cobertura mínima pero no les obliga a la cobertura máxima

si no tuvieran esta cobertura a través de itelazpi no podrían acceder a determinados sistemas de comunicación sean privados como es el caso de muchas

en sus justos términos es una red de comunicación que hace falta es una red de comunicación pública

que no tiene que ir a inversiones costosas excesivas porque en cualquier caso si lo hiciera tendría que salir de los recursos públicos por lo tanto si hay patrimonio si hay bienes

si hay espacio para poder desarrollar este tipo de empresas esto hay que hacerlo aunque efectivamente hay que hacerlo en colaboración con las instituciones

alberga cincuenta y ocho centros de esta red de los doscientos quince que hay en euskadi en álava hay un acuerdo como he citado antes donde participa la diputación foral de álava con el gobierno para el desarrollo de esta red pero al cual y según el propio convenio

colaboración y participación y esto ciertamente no se ha hecho

un conflicto entre administraciones que debemos de verlo

que hay que ver cuando los problemas son así no estamos ante una situación en la que alguien esté obteniendo un trato de favor para hacer un gran negocio y tener un gran lucro y del beneficiarse

un beneficio forma parte de los recursos públicos de esta comunidad otra cosa es si

de esos recursos públicos o puede haber más gestores mediante una fórmula conveniada yo creo que eso es lo que nos ha traído finalmente a este acuerdo

en esta cámara y también acordarlo yo creo que el acuerdo tiene un gran valor primero porque ha puesto de acuerdo a los cinco grupos parlamentarios de esta cámara pero en segundo lugar porque el acuerdo viene reforzado por la participación del gobierno también en ese acuerdo es decir también él ha querido poner su parte para que se llegara a este acuerdo

ya está dando también instrucciones a la propia empresa para que

que permita que esto se resuelva en las próximas semanas en los próximos meses yo creo que es acertado plantear que hay que

las entidades locales que en álava operan y que son esas juntas administrativas y que son propietarias

en sus términos es cierto que también prestan servicios a sus ciudadanos y por lo tanto que también necesitan obtener ingresos

compartir esos posibles ingresos en la medida en que pueda haber beneficios hay que compartir con esas instituciones

estamos primero ante una voluntad decidida de todos los grupos y también del gobierno para que haya ese diálogo para que haya ese de encuentro entre las partes estamos de acuerdo en que tiene que haber además transparencia sobre todo lo que se viene haciendo

los derechos y funciones que tiene esta empresa en relación con su ubicación y con todos los demás aspectos de negocio y esto también está contenido en la enmienda transaccional que hemos acordado

que debe haber una contraprestación de carácter económico lo cual ya además dibuja un poco la senda por la que hay que caminar para llegar a un acuerdo no se trata solamente un intercambio de impresiones y de tener mucho conocimiento sobre lo que está pasando sino que se trata también de poder resolver con contraprestación esto está así recogido en el acuerdo que hemos hecho entre todos

de este debate que nos trae hoy aquí es que esto se pone ya en marcha esto tiene ya acotado los términos en los que hay que intentar resolver este asunto

llevarnos a felicitarnos mutuamente porque es un problema que ha traído de cabeza durante muchos años

que como hemos visto en comparecencias que se han celebrado en este parlamento ha habido quien de forma desgarrada

negociar de acordar y le ha sido hasta hoy imposible pues estos representantes de estas juntas administrativas

su consideración y respeto en la forma de trabajar en el conjunto de la actividad pública a través de lo que hoy hemos

de solución y un cauce en cierto modo de tranquilidad y de horizonte para que

nos corresponde autofelicitarnos y disfrutar de esta parte del acuerdo pensando confiando esperando que

baina pozten gara decimos que no ha sido nada fácil porque ha habido unas posturas muy rígidas muy enrocadas

en todo momento y hasta este momento ha prevalecido unos intereses concretos

que debe defender el gobierno el gobierno como dijo aquí el sailburu hace tres semanas en respuesta a una interpelación

no puede ser otra que garantizar que

queden garantizados y nunca pueden estar en peligro por las aspiraciones concretas

de unas entidades locales unas administraciones públicas concretas se ha hablado de que la sensación de un abuso un abuso de una administración de un tamaño más grande sobre unas administraciones menores

en ningún caso cada administración ha defendido legítimamente los intereses que defiende con conocimiento y respeto institucional siendo la lealtad siempre recíproca tampoco ha habido desconocimiento del entramado institucional singular que tiene araba y nuestro partido

entramado institucional por lo tanto hasta ahora habiendo prevalecido unos intereses parciales sobre unos intereses generales no se podía aceptar sin embargo

se entendía que la pretensión fundamental de las juntas administrativas era una cuestión económica igual lo importante no era el final

tal como pudimos saber de la presidenta de la junta administrativa de la comparecencia que tuvimos el lunes en comisión

sin embargo igual debido a un mal asesoramiento por un asesoramiento sesgado pues se habían enrocado en unas fórmulas

recoge con equilibrio los intereses de todas las administraciones públicas en juego

del gobierno vasco ha sido y es ajustada a derecho

se ha mantenido la legitimidad de la ocupación de los montes de utilidad pública se mantiene la legitimidad existe esa legitimidad de ocupación cómo señora goirizelaia

en esas torres que están desde el año sesenta y seis y que hasta el año ochenta y cinco

a la diputación foral de araba cómo se puede cuestionar la legitimidad de esa ocupación cómo se puede cuestionar que el gobierno no tenga legitimidad en el ejercicio de sus competencias

a través de unos bienes de dominio público eso es incuestionable

la legitimidad o la no procedencia de que esta

siempre se ha mantenido que esa no era la fórmula que esa no podía ser la fórmula no obstante como se ha dicho hemos podido conseguir que sea que al final la aspiración era una aspiración económica y no tanto centrada en la fórmula con lo cual se ha aceptado el tema de la compensación económica como dijo el sailburu aquí también la actuación del gobierno

políticos que han pasado por las responsabilidades de gobierno tanto por la dirección de itelazpi como

repitiendo sus palabras la actuación de itelazpi no ha sido ni novedosa ni caprichosa

de diálogo y de acuerdo eso no es algo nuevo lo único había que las partes estaban enrocadas en sus posturas y no había posibilidad

ha existido siempre nosotros nuestro grupo ha participado en la elaboración de este

estamos satisfechos como hemos dicho la fórmula era

podía dar a las partes podía darles a las partes un acuerdo cerrado tenía que haber margen de negociación

no es aplicable es un concepto jurídico no aplicable cuando se trata de bienes de dominio público

que cómo íbamos cómo se va a someter la red de comunicaciones de euskadi a un plazo cómo se va a poner en peligro la subsistencia de la red de comunicaciones de euskadi por lo tanto la concesión no podía ser la

eso con lo cual ha habido la posibilidad de avanzar y de llegar a un acuerdo tenemos que poner en valor las funciones públicas que desarrolla itelazpi porque parece que

al resto de grupos pues parece que no sé

en esas torres tan que ha enseñado la

entre otras funciones que en ningún caso podrían recaer en manos privadas por otro lado se da a la población servicios relacionados con el derecho fundamental a la información como son la televisión

nunca se ha negado que todo sea que todo encaje estrictamente en el concepto de servicio público eso nunca se ha dicho además el servicio

y no se dice eso y además a la ciudadanía no le interesa si es un servicio público estricto a la ciudadanía lo que le interesa es que todos los servicios lleguen a todas las casas en todo lugar y en todo momento y con esa función con esa función de beneficio social es con la que

tampoco se ha ocultado en ningún momento que se albergan operadores privados de los cuales que por cierto por obligación legal del artículo noventa y cuatro de la ley general de telecomunicaciones esos

a itelazpi según ha avalado el informe de la comisión del mercado de telecomunicaciones del año dos mil trece que consta en esta cámara con lo cual

pero ajustado a la legalidad además no quiere decir que por tener esos beneficios por tener esos ingresos todo sea beneficio muchos de los centros

y si itelazpi si una sociedad pública una red pública no se encargara de esto esos servicios no llegarían a toda la ciudadanía por otro lado también con estos albergamientos de operadores privados se consigue un menor impacto ambiental

según un documento del departamento de medio ambiente a tres de cada cuatro vascos les interesa les preocupa especialmente la protección del medio ambiente con lo cual también tenemos que poner en valor esto por lo tanto vemos positivo el acuerdo porque se han flexibilizado posturas pero tenemos que tener claro que debe garantizarse siempre la existencia de la red pública de telecomunicaciones de euskadi

agradecer especialmente la flexibilidad que ha mostrado el departamento del gobierno y la sociedad pública itelazpi para poder llegar a un punto de encuentro también agradecer al resto de grupos